entiendo yo es que esta proposición de ley que presentamos tres grupos de la cámara en realidad no pertenece a ningún grupo de la cámara sino que pertenece y proviene de quien deberían de provenir casi todas las iniciativas legislativas

y de los sufridores o benefactores o beneficiarios en este caso del derecho civil foral

y hace ya unos cuantos años se aprobó la ley tres barra noventa y dos de derecho civil foral del país vasco hace ya más de veinte años

que se han comprobado por los afectados que son los ciudadanos la real sociedad bascongada de amigos del país comenzó los trabajos hace ya

esos trabajos los continuó la academia vasca del derecho

del colegio de bizkaia y por citar a dos personas evidentemente

que es uno de los impulsores de este proyecto y por supuesto también andrés urrutia que es otro de los continuadores

viene de la apreciación de los profesionales de los ciudadanos afectados y por lo tanto nosotros

y presentarlo como propuesta para que este parlamento lo apruebe yo quiero explicar alguna de las cosas que se plantean que son novedosas y que como todo derecho civil que afecta a la gente

cuando hay modificaciones hay que explicarlas muy bien para que todo el mundo se entere porque a veces cambian cosas y la gente piensa que esto es así y resulta que no es así sino que es de otra forma

efectos que pueden no ser los deseados

esta nueva ley que proponemos se basa en los principios que han inspirado siempre el derecho foral

se basa en el principio de la libertad tiene cincuenta la jurisprudencia

sentencias que hacen jurisprudencia en esta materia y hay que partir de la base de que ese principio

se tiene se ejerce o no se ejerce y cada uno puede hacerlo siempre hemos tenido el problema de la vecindad a la hora de aplicarlo

parece que lo vamos a resolver se crea la vecindad civil vasca común y evidentemente se mantienen las vecindades específicas territoriales

desaparecen los derechos forales en cada territorio se respetan el código civil se respeta el dictamen del consejo de estado número mil quinientos treinta y siete barra noventa y dos

y el nuevo sistema de vecindad civil es el punto de conexión

se ha tomado en consideración también en otras comunidades autónomas en esta materia como puede ser valencia cataluña baleares andalucía o aragón es evidente

para aprobarlo y se mantienen las vecindades territoriales porque se mantienen como no podía ser de otra forma

pues evidentemente la libertad de testar o el usufructo poderosos se mantiene

y en la guipuzcoana el régimen de transmisión del caserío en gipuzkoa como especificidades en derecho civil en el país vasco

por matizar las modificaciones más importantes vienen en sucesiones se puede acceder a la herencia

intestada y a partir de ahora además de en bizkaia por pacto sucesorio o por poder testatorio es decir se difiere la posibilidad de adquirir una herencia se mejora sustancialmente cómo queda

en caso de que no haya testamento y se reduce

se reducen las legítimas las legítimas en bizkaia en la ley vigente a día de hoy es de cuatro barra cinco esa legítima va a quedar en uno barra tres en el resto de territorios en álava

que son las que corresponden con el código civil también van a quedar reducidas a uno barra tres y por lo tanto

todos los vascos van a poder disponer libremente de dos barra tres al margen de los herederos forzosos que quedan reducidos a uno barra tres

y la otra salvedad evidentemente es en ayala

total de testar y por lo tanto no hay ninguna legítima que opere en ese territorio

como legitimario el derecho de habitación en la vivienda conyugal y por supuesto la posibilidad de hacer el testamento por comisario que impide que los herederos forzosos en este caso los hijos o los padres pudieran tener preferencia sobre

matrimonial vamos a tener tres regímenes comunes quedando bien claro que evidentemente las parejas sean matrimoniales o sean de hecho pueden establecer el régimen que ellos quieran mediante capitulaciones matrimoniales pero en defecto de hacerlo

la comunicación de bienes en el resto el régimen de gananciales tal y como está establecido en el código civil y en el caso de parejas de hecho el régimen digamos

el régimen de separación de bienes y en cualquier caso siempre cada una de las personas o de las parejas va a poder modificarlo y adaptarlo

convenientes como novedad se crea la comisión de derecho civil vasco como órgano

y en conclusión lo que yo creo que es más beneficioso para todo el mundo que quiera ejercerlo es que todos los vascos van a tener más posibilidades de decidir ellos lo que ellos quieran todos van a tener más instrumentos algunos

y hoy van a poder ejercitarlos o no el que quiera seguir como está puede hacerlo

de toda la cámara a esta proposición de ley que repito lo hemos firmado tres grupos pero en el fondo es una proposición de ley que viene de las personas afectadas
en este caso por el derecho civil vasco muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna

garrantzitsua da los debates apasionados que por motivos obvios suscita lo público en nuestro país

la importancia que el derecho civil tiene en el día a día de la ciudadanía hoy en este parlamento estamos dando un paso importantísimo para la sociedad vasca

nos lo van a agradecer todos los operadores jurídicos del país puesto que estamos respondiendo a una petición largamente demandada además

integrar las normativas europeas de un modo adecuado no voy a repetir lo que ha dicho el anterior portavoz y simplemente creo que me voy a limitar a leer uno de los puntos que aparece

criterio del gobierno que me parece que resume muy bien el contenido de la ley dice la proposición de ley realiza una ponderada y acorde con los tiempos labor de desarrollo del acerbo del derecho civil vasco que aparecía recogido en las leyes

y tres barra mil novecientos noventa y nueve de veintiséis de noviembre de tal manera

pero con la vista puesta en el derecho aplicable hoy en los ámbitos vasco estatal y de la unión europea y así se contemplan también en esta proposición de ley novedades significativas y oportunas que merecen ser destacadas por ejemplo

pero respetando al mismo tiempo las especialidades jurídicas propias de cada uno de los territorios históricos con una regulación más detallada y actualizada de las mismas la introducción de la vecindad civil vasca la extensión de su normativa a las parejas de hecho

de una comisión de derecho civil vasco como órgano consultivo del parlamento y gobierno vascos que pueda promover investigaciones sobre la materia y en su caso proponer

hoy damos curso iniciamos este proceso de modificación legislativa de tramitación de este proyecto de ley por cierto altamente demandada por todos los operadores jurídicos que afecta al derecho civil foral vasco

y que recoge por primera vez como ya ha manifestado el representante del grupo popular un concepto una institución clara y sobre todo útil la de vecindad civil vasca que va a determinar la ley aplicable y pretende atender debidamente a la resolución

y señorías lo hacemos además desde un amplísimo consenso con mucho trabajo con diálogo con debate escuchando todas las posiciones

y tras un estudio pausado en esta misma cámara los socialistas vascos queremos destacar esta cuestión

insustituible del acuerdo para mejorar las cosas que nos afectan a todos todos los días porque señorías todos los días se celebran matrimonios se establecen regímenes económico matrimoniales todos los días se otorgan testamentos

etcétera y ello con el objetivo de adaptar nuestra tradiciones

han transcurrido señorías más de treinta años desde que la constitución primero y el estatuto después reconocieron a este parlamento la competencia exclusiva en la conservación

pero ha sido la propia experiencia legislativa y la jurisprudencia del tribunal constitucional quienes han terminado por sentar las bases del reconocimiento de nuestras capacidades normativas en materia de derecho civil foral hay que señalar además que aunque con la ley actualmente vigente se ha logrado un hito importante desde el punto de la vista de la normatividad

hay que señalar que este proyecto pretende sobre todo actualizar nuestra instituciones como decía al siglo veintiuno

del siglo veintiuno este proyecto legislativo llega además a partir de una demanda muy importante como decía de los propios operadores jurídicos que reclamaban del legislador

hace dos legislaturas señorías este parlamento ya trabajó esta necesidad y en la pasada

visiones y posiciones de actualización que tenían esos mismos operadores jurídicos y el mundo académico eso dio lugar a que mi grupo en una de las primeras iniciativas en esta legislatura propusiera crear un foro de trabajo que culminara esa tarea de contraste y culminará en una propuesta

nuestro voto afirmativo en aquel debate señorías hubo un incomprensible reproche sobre el hecho de que tomáramos la iniciativa pero hoy más que nunca

no parece que la nuestra fuera una mala idea que la propuesta se trabajara ya directamente desde este parlamento

con las aportaciones que quieran plantear todos los grupos pero el amplio acuerdo en el origen así como haber contado previamente con quienes tendrán que aplicar

que la aprobación definitiva no se vaya a demorar demasiado así que termino por donde empezaba con esta proposición de ley recuperamos

igualdad de derechos y obligaciones para todos los ciudadanos y ciudadanas vascas con independencia de su lugar de residencia su capacidad económica o de su ideología en el proceso de construcción

que avalen esa igualdad sin renunciar a las peculiaridades y tradiciones de eso señorías hablamos en este texto hoy avalamos desde un amplio consenso esa idea y esperamos que en los próximos debates sigamos compartiendo ese criterio común y en definitiva pergeñemos una ley

privado vasco garantizando certezas igualdad y seguridad jurídica a toda la ciudadanía vasca ese y no otro es

horixe da kontua votamos a favor de tratar esta proposición de ley pero tenemos más dudas que certezas tenemos voluntad real de desarrollar el derecho foral vasco hasta la consecución de un verdadero civil vasco queremos hacer de lo histórico actualizado queremos hacer de lo fragmentario algo unificado o por el contrario queremos preservar un arcaísmo una reliquia

siempre menguante siempre en merma queremos hacer un país también desde el derecho privado queremos empoderarnos como ciudadanos y ciudadanas que buscamos en el derecho civil la resolución de conflictos actuales

queremos realmente un código civil vasco o a caso este es un proyecto demasiado ambicioso es demasiado pedir creemos que no creemos que no porque además de esta propuesto también tenemos sobre la mesa otra propuesta nos mueve en este sentido hagamos compatible esta ley con esa otra propuesta más ambiciosa de hacer realmente un código civil

inmediatamente modificada y desarrollada si se prefiere desbordada en sus estrechos límites en su fragmentación territorial en su reducido contenido esta ley debe incluir y dar coherencia a leyes ya existentes o que pronto existirán de derecho civil vasco la ley de parejas de hecho la ley de asociaciones la ley de cooperativas la ley vasca de custodia compartida etcétera esta ley debe constituir instituciones de derecho civil actuales

amaitzen dut esta ley debe vertebrar país

en el proyecto que hoy se nos presenta no vemos reflejado eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna gai zerrendako hirugarren puntua euskal

sí gracias señora presidente buenos días señorías desde el presentamos la siguiente proposición de ley para su toma en consideración referente a la defensa de la calidad de la viña y el vino

seguro que todos coincidimos en reconocer el peso específico que la producción vitivinícola posee dentro del sector agroalimentario vasco

especialmente dentro del territorio histórico de álava en el país vasco contamos con las denominaciones de origen txakoli de gipuzkoa

y la denominación de origen protegida de rioja en rioja alavesa estas denominaciones de origen cada una de ellas con sus especificidades

orientar sus producciones con criterios de calidad mejorar la calidad es el esfuerzo que cada día los productores y las administraciones se fijan de ahí los buenos resultados que nuestros vinos tienen tanto a nivel nacional como internacional además de ir forjando en torno a la figura de la viña y el vino la cultura vitivinícola la preservación de la calidad del vino y la viña a través de sus denominaciones de origen derivado de la estrecha vinculación de la calidad de nuestros viñedos y vinos o dicha figura exige que en el ámbito de la comunidad autónoma del país vasco el viñedo

por destino exclusivo la producción de vinos basados en estos sistemas de calidad son varias las ocasiones que en esta cámara

ya que permitió que se pusiera fecha de caducidad a los derechos de plantación esta fecha es el treinta y uno de diciembre de dos mil quince

ya que una mayoría de estados miembros no estaban interesados en esta posición la comisión europea ahora en vísperas de esta liberalización

o cuando no una denominación de origen está en riesgo significativo de depreciación

lo que significa que asume que puede haber depreciación algo que ya intuíamos hace años cuando se aprobó

esta decisión en la comisión europea el reglamento establece nuevas autorizaciones de plantación o replantación

a nuevas plantaciones y considera o puede considerar que no existe riesgo si esas plantacionesvan destinadas a viñedo para vino de mesa esto supondría un grave riesgo para nuestras denominaciones de origen una depreciación de la calidad y prestigio conseguido con mucho esfuerzo del sector vitivinícola y de las administraciones el estatuto de autonomía para el país vasco aprobado por la ley tres barra mil novecientos setenta y nueve de dieciocho de diciembre en el artículo

competencia exclusiva en materia de agricultura de acuerdo con la ordenación general de la economía

la competencia exclusiva en denominaciones de origen en colaboración con el estado es en base a esto por lo que presentamos esta proposición de ley en defensa de la calidad

uno establece diversas medidas para adoptar a la nueva regulación comunitaria con el fin de garantizar que en el territorio de la comunidad autónoma del país vasco

a la producción de vino que se pueda comercializar a través de una figura de calidad y el artículo dos medidas para la protección de la variedad genética de la vid de nuestra comunidad autónoma proteger y mantener el esfuerzo de los poderes públicos en relación con las variedades genéticas de la vid así como fomentar las actuaciones desarrolladas por los productores por los viticultores para mantener el viñedo antiguo como una expresión más de la tradición

que el sector vitivinícola arropa estas medidas porque entienden que es necesario utilizar las herramientas que están a nuestras manos para proteger la calidad de nuestros vinos y viñas así lo han expresado reiteradamente en los últimos meses el gobierno

aunque dice que tal vez debería ir incluida en la ley de ordenación vitivinícola nosotros no tenemos ningún problema en que así sea por lo tanto no será un motivo de discrepancia

no nos oponemos a ello por lo tanto lo valoramos inicialmente como algo posible también dice que tendrán que ser

cosa que no tenemos ningún problema y también nos parece que si es interesante de todos aquellos que participemos en el debate

de esta proposición de ley si hoy es aprobada su toma en consideración podamos pedir aquellas comparecencias que tengamos

yo les invitaría a que voten a favor de esa toma en consideración para un debate y aprobar unas medidas que lo que piden o lo que pretenden es proteger la calidad de nuestros vinos y nuestras viñas nada más muchas gracias

porque sí nos parece muy interesante tomar la decisión legal de proteger nuestro viñedo y nuestro vino alrededor de marcas de calidad

no obstante independientemente de que pueda parecer esta proposición de ley una acción

electoral puntual no podemos olvidar que deviene de la modificación que ya se ha explicado en la política agrícola de la unión europea que está haciendo desaparecer a gran velocidad las organizaciones comunes de mercados

para poder proveer de una manera sostenible los mercados en un proceso liberalizador francamente acelerado y que no sabemos a dónde nos va a llevar y de que

a tapar de alguna manera un chorro que se nos escapaba

vemos que el fondo aunque es corto en la forma el fondo es grueso el fondo es importante

pero sí entendemos y en eso estamos de acuerdo con el criterio del gobierno que no parece oportuno que

habría que buscar una manera técnicamente o jurídicamente que permita que esto pueda ser

de la vitivinicultura y de la ordenación jurídica de la vitivinicultura en la comunidad

también es cierto que por la diferencia de tramitar una ley desde el gobierno vasco que lleva una enorme complejidad que si cojuas que si informes

parece que se pierden en el camino un montón de informaciones y de debates que entendemos que son imprescindibles en ese sentido creemos que en la ponencia que se cree

de esta ley son las que van a tener que gestionar esta ley hay que llamar a las asociaciones sectoriales para que debatamos conjuntamente a ver

cómo lo vemos si vamos por el buen camino o no por tanto es una ley que requiere de un debate previo aunque solo tenga uno o dos artículos pero insisto el fondo es muy potente

con esta ley presentada en otras comunidades autónomas a lo mejor se ha obviado un cierto reparto competencial

a nosotros nos cabe la duda de si el gobierno no es quien debería de otorgar determinadas subvenciones al viñedo o no que

en cualquier caso hay detalles técnicos que habrá que debatir en la ponencia y por tanto desde nuestro punto de vista y entendiendo que hay que restringir la producción vinícola en euskadi a las denominaciones o

y no abrirlo a otro tipo de cosas que ese es el debate tampoco creemos que estrictamente

de diferente orden en ese sentido vuelvo a reiterar nuestro grupo va a votar afirmativamente a esto y al mismo tiempo anunciamos que esperamos
también un consenso de los grupos para poder debatir a fondo esta proposición de ley en la ponencia muchas gracias eskerrik asko telleria jauna

maneiro no vas a tomar la palabra no no fresnedo zurea da hitza no va a tomar la palabra

pero para hacer una ley bastante mejor de la que nos propone el pp votamos hacer lo que la mayoría absoluta del pp

cuya copia nos traen hoy aquí votamos para hacerlo porque efectivamente tenemos que consensuar con nuestras denominaciones de origen y nuestras tres diputaciones forales compartimos la necesidad de que en euskadi

destinadas a elaborar vinos de mesa compartimos

y su esfuerzo por evitar plantaciones masivas y especulativas que pongan en riesgo el prestigio y el buen hacer constatado históricamente pero eso

no lo compartimos en otros foros porque ha sido el impuesto de los populares por lo que bruselas ha dejado de amparar a nuestro rioja la liberalización del viñedo que intentamos corregir con esta ley

impulsada por el grupo popular europeo por ello porque el pp europeo ha dejado desprotegido a nuestro vino de calidad

hemos propuesto reformar en las cortes la ley de denominaciones de origen buscamos un amparo superior al que nos proporciona la ley que resulte de la tramitación que ahora iniciamos en correspondencia parece lógico que de acuerdo con el espíritu del grupo hoy proponente y de la preocupación que dice manifestar los populares por una vez podrían atender

desde la oposición en madrid y aceptar nuestra propuesta aquí se medirá la sinceridad del pp de euskadi con su iniciativa por tanto

de una ley que impulsa el pp para corregir las torpezas del pp las torpezas que ya decíamos los socialistas las alertábamos que veníamos denunciando el riesgo de la desaparición de los derechos de plantación y la necesidad de proteger la denominación de origen

a la liberalización favorecida por el gobierno de rajoy en bruselas estaría bien

a las últimas que está acumulando por los errores de su mandato los socialistas vamos a apoyar aquí

las medidas de protección de nuestros productos la variedad genética de la vid en nuestra comarca de rioja alavesa y en nuestra comunidad autónoma y vamos a fomentar la investigación y establecer líneas de ayudas

perseveración del viñedo antiguo en nuestra comunidad y en especial en nuestra comarca de rioja alavesa con este voto favorable damos continuidad a nuestro apoyo al sector vitivinícola a nuestra apuesta por una estrategia de

que existen y diferentes de los demás por realmente su gran calidad muchas gracias eskerrik asko

en un referente integral y mientras se ejecute la negociación hori egintzat ematen dugu hori bideratuko da orain edo

eta agian behartuak egongo zarete baina kontuz denbora aurka daukagu mientras se ejecute la negociación que el parlamento aprobó acelerar la integración funcional mediante la creación de equipos conjuntos de trabajo procedentes de ambos hospitales tanto en aquellas áreas que ya han alcanzado protocolos comunes

entre ambos centros y para ello abrir la posibilidad de usar los espacios y servicios del instituto onkologikoa

donostia priorizando y mejorando así este espacio y los usos públicos del instituto onkologikoa y reforzando su beneficio social iruditzen zait hori zentzuskoa eta oso logikoa dela bigarren puntua con la finalidad de facilitar una integración no traumática y ágil además de incrementar los espacios comunes de trabajo que permita la conciliación de las culturas de trabajo

como del instituto onkologikoa que osakidetza defina

un plan estratégico en el plazo de tres meses bajo la dirección de los responsables de los servicios médicos de ambas áreas beraz akordioa bilatzen dugu

azkartzeko eta laguntzeko retirar el límite de financiación anual al convenio suscrito entre la fundación kutxa y el departamento de salud

señorías hoy no vamos a proponer la integración del hospital oncológico

eso ya lo hemos debatido y votado hasta en dos ocasiones en este pleno aprobándolo desde luego hoy lo que debatimos es el camino que deben de tomar

integrantes de este proceso de fusión como son por un lado el departamento de salud y por otro lado el oncológico para alcanzar ese futuro común de los servicios oncológicos del hospital universitario donostia y el instituto onkologikoa para ello necesarias varias actuaciones desde el departamento de salud la primera de ellas romper el techo de los veintitrés millónes cien mil que abona

al oncológico independientemente de los servicios que preste este claro si prestara de menos diríamos que estaba financiando una actividad no realizada lo cual no sería correcto pero es que ocurre al revés el oncológico realiza bastante más trabajo del que es financiado

de hecho en sanidad nos explicaron tanto la directora gerente del oncológico como el responsable de la fundación kutxa que ya en el año dos mil catorce

ustedes creen que eso es razonable que el departamento de salud se esté financiando del oncológico el departamento de salud está recibiendo una financiación injusta empobreciendo de esta manera al oncológico

este parlamento no debe admitir porque el oncológico no puede decir no

cuando ha cubierto el techo de su financiación el oncológico recibe todos los pacientes que le envía el departamento de salud y

ese es el tema por otro lado creemos que debe además de romper el techo de los veintitrés millónes y financiar toda la actividad

por el oncológico para el departamento de salud todos debe de abonarlos creemos que debe incrementar y acelerar los proyectos de integración funcional de ambos equipos oncológicos para lograr de un modo no traumático de un modo que se vayan uniendo las culturas de ambos hospitales para lograr la fusión definitiva también creemos que debe de impulsar donosti ocupe espacios libres en el oncológico en favor del servicio de oncología y otros servicios complementarios para mejorar el tratamiento integral que necesitan los pacientes oncológicos de esta manera se aprovecharían los espacios libres del oncológico mejorando la eficiencia de este

espacios disponibles para otros servicios que también mejorarían la oferta y la eficiencia de servicios que ofrece donosti por ejemplo la utilización del nuevo hospital de día oncológico que se ha realizado en el instituto oncológico permitiría

hospital de día oncológico para dedicarlos a hospital de día genérico

hay posibilidades que mejorarían la eficiencia de ambos hospitales desde luego se notaría inmediatamente en las listas de espera estas decisiones generarían en el oncológico

sin necesidad de buscar contratos con empresas privadas desvirtuando la función y la misión

y que nunca fue objeto de la obra social miren ustedes los

onkologikoa nació para atender a las personas que sufren cáncer y para investigar

por muy importante que sean ambas patologías y con todo el respeto para quienes la sufren y a los doctores que se ofrecen para tratarlas porque la pregunta no se la hacemos al departamento de salud sino en este caso

qué tiene que ver con la obra social hacer liposucciones en el oncológico

y esto si que va como obligación al departamento de salud es la responsabilidad de los poderes públicos en euskadi la oferta de los servicios sanitarios

ya no es una necesidad de una obra social ofertar servicios sanitarios puesto que los poderes públicos asumen dicha obligación finalmente decir que la sociedad ha evolucionado mucho desde que en el año mil novecientos cincuenta y dos inició su andadura el oncológico mediante

así como de las cajas de ahorros municipal y provincial hoy las necesidades sociales prioritariamente son muy diferentes a las sanitarias

los poderes públicos por tanto a estas necesidades sociales hoy prioritarias en la sociedad

si abandonara la obligación de sostener el oncológico podría dirigir toda su actividad y financiación a otras actividades sociales como podrían ser dirigidas

en aquellas necesidades no cubiertas por los poderes públicos o dirigirse a cubrir las necesidades en materia de pobreza energética

también son tan necesarias o a la vivienda temporal de inclusión social en definitiva

ni el departamento de salud está haciendo los deberes en este asunto ni la fundación kutxa está respondiendo a la responsabilidad que tiene hoy con la sociedad guipuzcoana por todo ello hemos firmado un acuerdo con el grupo eh bildu que creemos que podríamos ser perfectamente aceptado mayoritariamente en este parlamento

diagnóstico investigación y tratamiento del cáncer es un centro monográfico y constituye un claro referente en atención oncológica con

y un equipo humano formado por excelentes profesionales creo que es de justicia volver a poner hoy en esta cámara el valor el servicio que presta a la población guipuzcoana y al

el oncológico y poner también encima de la mesa el reconocimiento que tiene

que lo asumió como obra social en mil novecientos cincuenta y dos

fundación sin ánimo de lucro cuya actividad se limita a tareas de interés público cumple una función pública por tanto aunque titularidad no sea pública desde hace más de veinte años hay suscrito un acuerdo de colaboración con el departamento de salud y así se define un papel del oncológico en la red sanitaria de euskadi el último

renovado para este año en virtud de este concierto se garantiza el ochenta y cinco por ciento de la financiación

de veintitrés coma uno millónes de euros al año en virtud del concierto onkologikoa se hace cargo de los pacientes

y de otros lugares de euskadi también a la vez hay que decir que atiende a pacientes procedentes de seguros privados y particulares

el oncológico es un recurso más dentro de la oncología pública y desempeña un papel complementario dentro hay que decir de un modelo de atención único de oncología en el partido popular consideramos que tanto el oncológico como el hospital universitario de donostia son instituciones

y que por lo tanto el camino es la colaboración la coordinación entre los dos centros que deben de dar respuesta una única respuesta a los enfermos homogénea

en consecuencia la planificación de la actividad oncológica debería realizarse como digo de forma conjunta y coordinada entre los dos centros creo que la integración funcional a la que se ha aludido en estas intervenciones en el sentido de aprovechar las sinergias entre los centros se está produciendo

por eso hemos presentado una enmienda en la que pedimos un análisis al gobierno de que se haga un análisis concreto de cómo se está ejecutando ese plan de integración funcional pero

la aspiración que ustedes o la pretensión que ustedes han planteado en anteriores debates que es la integración en la red pública de

se está produciendo como se nos ha explicado aquí en numerosas comparecencias por

eso sí por fases y un proceso que culmina con un calendario prefijado que culmina dos mil diecisiete así en el año dos mil doce ya se constituyó un grupo de trabajo con profesionales de ambos centros y del departamento de sanidad y el objeto de la constitución de este grupo de trabajo era reflexionar sobre la atención

e identificar posibles ámbitos de mejora y se concluyó que la mejor opción era la integración funcional y esas conclusiones se han plasmado en un documento

anteriormente se da una atención mas homogénea a los pacientes

de los recursos evitando las duplicidades que puedan

hablamos de que ya es un hecho la integración oncológica en los servicios de radioterapia y radiofísica que hay una gestión única de las listas de espera que también esta integración abarca la distribución de pacientes entre distintos centros en función de las patologías

a estas distintas patologías concretas la integración de los sistemas de información

de todos los pacientes que precisan radioterapia la renovación de los equipos también es una cuestión importante y creo que es una cuestión a la que obviamente se tendrá que atender porque es una prioridad estratégica y así se adquirió el compromiso por parte de los

que comparecieron en esta comisión también hemos tenido la comparecencia del consejero para dar explicaciones sobre el nivel del cumplimiento del

en este debate que la integración funcional para nosotros es una cuestión básica

el hospital universitario de donostia con su servicio de oncología y onkologikoa creo que ese el camino que ese es el camino que se ha emprendido y creo que es el camino

óptimo y el que obviamente está funcionando y el que garantiza el futuro de la atención oncológica en gipuzkoa y también la atención oncológica dado que es un referente la atención en onkologikoa y a la atención que se está haciendo que se da de forma

a los pacientes con cáncer al resto de pacientes del país vasco nos parece importante que por parte del gobierno vasco se siga garantizando

los compromisos adquiridos de financiación para que la financiación sea suficiente y estable y en ese sentido se garantice la estabilidad en el futuro

y también nos parecía oportuno llegado este momento en el que se está produciendo por fases esa integración funcional de acuerdo a un calendario de acuerdo a un plan aprobado después de las conclusiones de ese grupo de trabajo al que hacía referencia que se haga un análisis

de los servicios de oncología en los dos centros con la evaluación de los aspectos ejecutados y también con un cronograma de actuaciones futuras

que se conozca y por eso hemos instado a que se haga esa evaluación y ese cronograma de posibles actuaciones futuras hay una enmienda de transacción a la que se ha hecho referencia aquí creo que al final

de transacción subyace la misma pretensión de los grupos que apoyan la integración en la red pública

antes de que se ejecute la negociación

pretensión a la que he hecho referencia de la integración en la red pública

desarrollándose sí que creo conveniente que podamos conocer una evaluación del mismo y las actuaciones futuras y en ese sentido lo hemos recogido en esta enmienda de transacción

que hace dos meses tuvimos en esta cámara por segunda vez y en consecuencia defenderemos la enmienda que acabo de señalar con los dos puntos

estos dos años y medio de legislatura se están repitiendo permanentemente determinados debates sobre esta cuestión ya hemos debatido en varias ocasiones por lo tanto tampoco hay nada nuevo que decir de hecho ya se aprobó en su momento una moción relativa a esta cuestión a través de la cual se le pedía al gobierno que

en la red pública de osakidetza y ciertamente este gobierno ha incumplido permanentemente ese mandato parlamentario nosotros hemos presentado una enmienda de totalidad que va nuevamente

es lo que seguimos defendiendo y los argumentos son los que siempre hemos defendido que no vamos a repetir hoy pero que alguno de los portavoces o algunas de las portavoces que me han precedido pues ya han planteado por lo tanto nuestro propósito es votar nuestra enmienda de totalidad

una transaccional entre el grupo socialista y eh bildu no sé si con ese objetivo de que no salga adelante

nosotros en todo caso nos hemos mantenido al margen de esas negociaciones y votaríamos por lo tanto nuestra enmienda

solo cabría esperar que el gobierno cumpla los mandatos parlamentarios y en concreto los mandatos parlamentarios referidos a la cuestión del oncológico

bidea jorratzen ari zela por lo tanto

este concierto ha dotado de estabilidad económica y ha garantizado por lo tanto la supervivencia del centro

pero además este hecho posibilitó poder ir dando pasos para profundizar en la integración funcional

a día de hoy sigue perteneciendo a la obra social de la fundación kutxa y que sepamos nadie ha manifestado la intención de desprenderse del centro ni siquiera el representante del partido socialista ha manifestado ninguna voluntad de que el centro

se ponga a la venta en los órganos de dirección del propio onkologikoa tampoco ustedes cuando el partido socialista tuvo responsabilidades de gobierno

en ese sentido ni plantearon ninguna iniciativa en ese sentido

ni desde el gobierno hicieron ningún ademán para lograr ese objetivo

proposatzen ari zaretena proponen decisiones que debe adoptar

del patronato de onkologikoa tal y como está planteada vuestra enmienda

y que desde el parlamento se le va a instar a que lo haga vuelvo a reafirmar lo de antes guk uste dugu

gracias presidenta me voy a dirigir al representante del pnv en primer lugar porque creo qua ha señalado bastantes inexactitudes en sus argumentos primero

acerca de su criterio sobre el oncológico lo ha hecho a favor de la integración en la sanidad pública siempre que ha tenido que pronunciarse y votar lo ha hecho a favor de la integración del instituto oncológico en la sanidad pública y los problemas económicos del oncológico no empezaron en el once

una disminución de financiación en el doce pero es que en el once hubo decisiones equivocadas por parte de todos mire usted

escribió en el año once a los jefes de servicios del oncológico diciéndoles que trataran a los pacientes que provenían de la sanidad pública

y eso lo puso por escrito no fue una orden verbal lo hizo por escrito un error naturalmente porque ahora defiende la pública no tengo ninguna duda pero cuando cuenta usted cosas del dos mil once

luego dice que parece que queremos invadir los espacios del oncológico de ninguna manera proponemos nada que no se realice mediante acuerdo entre el departamento de salud responsable de ofertar los servicios sanitarios a la población y el instituto oncológico

está usted banalizando la preocupación que trajeron a la comisión de salud los representantes de los profesionales médicos profesionales sanitarios del oncológico que fueron los que señalaron que no estaba hecho el oncológico para hacer liposucciones y no vemos

sean servicios complementarios a la oncología como digo por muy problema que signifiquen para la población sean un servicio complementario oncológico

por cierto recordará usted que en comisión también el consejero se pronunció en contra de que o que no le gustaba que el onkologikoa

privada hacia otros servicios que no tenían nada que ver con la oncología por tanto no defienda usted cosas que no son defendibles tampoco por los representantes sanitarios más responsables precisamente

de la promoción de la planificación sanitaria en gipuzkoa por tanto insistimos el concierto actual

porque le pone un tope de financiación y no le pone un tope de trabajo porque ustedes saben muy bien pero

que es el que le ha obligado a buscar esa financiación privada en áreas que no tienen nada que ver con la oncología y que son a nuestro juicio decisiones que van en el sentido contrario de la integración funcional por eso insistimos que la solución debe ir por financiar todo el trabajo que se realiza en el onkologikoa para la sanidad pública

mejoraría la financiación del día a día del mantenimiento de los servicios oncológicos y liberaría recursos de la obra social para otras tareas

tan necesarias como son la renovación de equipos porque

con equipamientos nuevos de hace cinco años el señor consejero le explicará a usted perfectamente

y que toca renovar y a ver de donde va haber recursos

tiene que dedicarse al mantenimiento a ese quince por ciento de financiación que le basta que por cierto como digo tanto la gerente como el responsable de la obra social nos dijeron

de pérdida de servicios prestados a la sanidad pública y no abonados

un hospital que tiene problemas de financiación no se puede permitir el lujo de donar uno millón de euros a la sanidad pública por tanto insistimos

hacia servicios hacia la incorporación de servicios que no aportan nada a la oncología que no aportan nada a la integración funcional nada más y muchas gracias

un poco rigurosos yo creo que el proceso de integración tal y como se ha configurado de colaboración entre los dos

del hospital donostia y por otra parte el onkologikoa es fruto de un trabajo de un grupo de trabajo en el que estaban los profesionales de ambos centros y el departamento de sanidad por lo tanto creo que no improvisando en todo este proceso sino que hay un plan de integración funcional establecido con unas bases con unas fases y un calendario

por eso queremos saber cómo va ese proceso su evaluación

su posible ejecución de cara al futuro y eso es lo que recogemos en nuestra enmienda pero les vuelvo a repetir ustedes hoy están haciendo una serie de piruetas pero al final lo que pretenden es la integración del onkologikoa

lo que yo me pregunto señora roncal es por qué

la plantearon ustedes cuando tuvieron responsabilidades de gobierno hace unos años que precisamente era cuando onkologikoa

en ese momento era cuando ustedes si tenían esa pretensión como partido político de que onkologikoa se integre en la red pública de osakidetza la hubieran planteado es que fueron ustedes

del carácter que fuera espero que las decisiones en el ámbito de la sanidad se produzcan de acuerdo a los criterios y parámetros que deben corresponder a este tipo de decisiones ustedes fueron también en su gobierno cuando

que se producían a onkologikoa o sea ustedes también querían bajar la actividad de una forma deliberada vamos a utilizar esta

muy crítica y ustedes no plantearon la integración en la red pública de osakidetza por lo tanto creo que su discurso mucho no se sostiene

defender esta posición que es poco creíble porque ustedes cuando pudieron hacerlo y con responsabilidades de gobierno no defendieron sino defendieron todo lo contrario que cada

necesita otros servicios como la ginecología urología

desde hace mucho con empresas privadas también

la actividad no oncológica crecía en tasas superiores al diez por ciento es lo que decía la señora moreno en el año dos mil trece ocho mil setecientos diecinueve pacientes de otras mutuas

por lo tanto no se está haciendo algo diferente a lo que se ha hecho siempre

bestalde roncal andrea cómo dice que están obsoletos los equipos

cómo puede afirmar que los equipos son inferiores en el hospital universitario

no lleva ni dos años y medio parece que está asumiendo sí sí es lo que ha dicho usted lo que ha dicho usted que osakidetza para que se convierta en referente

parece que esta usted asumiendo que usted cuando dejaron el gobierno dejaron el hospital universitario de donostia con una dotación insuficiente

y aparte el tema de las anécdotas que se lo vuelvo a repetir ya se lo dijo el señor alberro el director médico del onkologikoa un poco de respeto un poco de respeto no se puede hablar tan a la ligera

con el cáncer de próstata no es necesaria la especialidad de urología en oncología

muy claros muy concretos konklusio bezala eta interbentzioetan esandakoa ere bai patronatuko ordezkariak esandakoa está garantizada la estabilidad económica la financiera

onkologikoa está más integrado que nunca en el sistema público vasco de salud

en cuanto a la financiación y lo que decía del millón de euros sí también le recuerdo que él no se limitaba al millón de euros él le explicaba

y que precisamente si él es el responsable que se debería de estar quejando de esta

y dijo que probablemente lo lógico es que se encontrara una solución a esta situación

sí gracias presidenta buenos días defiendo una iniciativa en defensa de la cultura en nuestra propuesta original proponíamos instar al gobierno de españa a establecer el tipo de iva reducido para bienes servicios y actividades culturales
isiltasuna mesedez así como a equiparar el iva del libro digital
del libro en papel y finalmente hemos llegado a una transaccional con el grupo socialista para que este parlamento pueda manifestar su rechazo a los altos tipos impositivos establecidos para los bienes y servicios culturales por considerar que alejan a la ciudadanía de la cultura y tienen un efecto claramente negativo sobre la economía

para bienes servicios y actividades culturales proponemos instar al gobierno de españa a defender en la unión europea los cambios legislativos y las actuaciones necesarias para equiparar

al iva del libro en papel y finalmente proponemos instar al gobierno de españa a proponer y defender

para la cultura armonizado con un tipo máximo inferior

reyes la posibilidad de firmar esta transaccional y finalmente la firma de este

el lunes nueve de marzo el mismo día en que forges publicaba una viñeta que ponía de manifiesto el nefasto efecto sobre la cultura producido por el actual iva cultural el diario abc

por parte del gobierno de españa sin embargo nuestra alegría duró poco ya que a las pocas horas el ministerio de hacienda anunciaba que no hay nada que anunciar sobre el iva cultural y el propio rajoy desde guatemala negó que se fuese a producir una rebaja cultural esta actitud se encuentra dentro de la tónica general que ha seguido el gobierno de rajoy cuyas actuaciones han provocado que la deuda se haya disparado hasta casi alcanzar el cien por ciento del pib

todavía escalofriantes y que se haya producido la mayor subida de impuestos de la democracia pese a la posterior bajada impositiva que no compensó la subida de dos mil doce el iva cultural en españa es del veintiuno por ciento

europea solo por detrás de hungría veintisiete por ciento y dinamarca veinticinco por ciento

es del cinco coma cinco por ciento y en noruega el cero por ciento en un periodo muy breve de tiempo el llamado iva cultural ha pasado del ocho por ciento al veintiuno por ciento ello ha supuesto un batacazo

se calcula que la subida del iva ha traído consigo un descenso del público que acude a representaciones culturales de alrededor del treinta por ciento

de recaudación la cultura es en españa literal y figuradamente un bien de lujo y en fin así nos va

su drástica reducción aquí se plantea básicamente el mismo problema de concepción que se nos plantea cuando hablamos

cuando hablamos de educación o cuando hablamos de gasto social la cultura la educación el gasto social

no pueden ser concebidas como un gasto si no que deben ser consideradas y concebidas como lo que realmente son una inversión absolutamente imprescindible que debe ser protegida por los poderes públicos observemos lo que ocurre en otros países de nuestro entorno en francia el iva cultural es del cinco coma cinco por ciento en alemania

el seis coma cinco por ciento en finlandia el diez por ciento en irlanda

el cero por ciento sirva al menos como datos referenciales

es sencillo de explicar porque estos países consideran la cultura como una verdadera inversión como algo imprescindible como algo a proteger por los poderes públicos

y la cultura en todo momento pero más aun si tenemos en cuenta el contexto socioeconómico actual debemos entender la cultura como una prioridad como uno de los principales objetivos de todas las políticas públicas nuestra música

nuestro teatro nuestra danza son cultura y la cultura es la base

humano alejar a los ciudadanos de la cultura es alejar a los ciudadanos del desarrollo este no es un problema que afecte únicamente al consumidor de cultura el aumento de este impuesto en trece puntos porcentuales hace casi inviables las producciones y esto tiene una gran repercusión sobre el empleo el número de actuaciones teatrales se ha reducido un treinta por ciento en euskadi más del ochenta por ciento del sector del teatro en euskadi está en paro la industria cultural genera en españa un gran número de puestos de trabajo más de medio millón

cerca del cuatro por ciento se está produciendo en este sector lo que ya está sucediendo en otros la fuga de cerebros de artistas técnicos y profesionales de la cultura y las artes ya en dos mil doce una consultora publicó un estudio

el cierre de cerca de novecientos salas y el despido de miles de empleados se han producido varias iniciativas a este respecto

que hay vida inteligente en los distintos parlamentos la cultura es un bien a proteger e incentivar

para nuestra economía estos dos aspectos hacen que nos mantengamos inquebrantables ante la necesidad de implantar

reducido mención aparte merece el libro en formato digital que a diferencia

es otro de esos productos casi de lujo que se consumen en españa de cada cien libros publicados en españa veintitrés son digitales y setenta y cuatro en papel es decir supone ya más del veintitrés por ciento de la producción

alcanzó en dos mil trece los ochenta coma tres millónes de euros representando el tres coma siete por ciento de la facturación global sin embargo

observatorio tecnológico del ministerio de educación cultura y deporte como la versión digital de un libro de papel

del veintiuno por ciento es otro de los asuntos que proponemos cambiar con esta iniciativa en la era digital mantenemos una diferencia sustancial entre el libro

en papel que no tiene ninguna explicación más allá de la meramente recaudatoria y que minusvalora la importancia del libro

y la cultura por lo tanto y en conclusión por el empleo

por el acceso a la educación y la cultura es necesario reducir

y el iva del libro digital para garantizar el derecho constitucional de acceso a la cultura

de promoverla de ahí nuestra iniciativa original y de ahí la transaccional firmada con el grupo socialista nada más y gracias eskerrik asko

eta argi dago eskuinak egin duena con la subida del iva en cultura el pp se vengó contra un sector que es un escenario abierto a la crítica libre contra el poder

libre biziko garen herri libre bat osatzea hori batetik gero bota zuen llevamos muchos años trabajando en los cimientos trabajando en unos cimientos sólidos para euskadi en unos cimientos capaces de sostener una gran casa y un gran tejado

porque todo este camino solo lleva a un destino a una euskadi próspera y dueña de su porvenir a una nación que quiere decidir su futuro sin ataduras

y seremos una estrella en europa solo quien sueña con lo imposible consigue hacerlo posible por eso es lícito soñar en euskadi gora euskadi askatuta horiek ortuzarren hitzak

cada uno intente arrimar un poquito el discurso a determinadas intencionalidades hemos oído hablar de venganzas

oído hablar de grandes estrategias nacionales de unos y de otros incluso hemos oído un gora euskadi askatuta un poco triste señora briñas creo para decir gora euskadi askatuta tendría usted que haberlo

de interés pero si me permiten hagamos

el tipo general del iva se encontraba en el dieciséis por ciento como ustedes conservan mientras que el reducido era el siete por ciento y el súper reducido era

en el año dos mil diez el gobierno del partido socialista decidió subir por primera vez desde mil novecientos noventa y cinco el iva general que pasó como ustedes recuerdan

al dieciocho por ciento el tipo reducido también experimentó un aumento desde mil novecientos noventa y cinco estaba en el siete por ciento y fue aumentado al ocho por ciento manteniendo igual que ahora

en el cuatro por ciento no hace falta que recordemos en qué situación económica se encontraba españa

situación económica que obligó también al partido gobernante entonces al gobierno del partido socialista a tomar aquella decisión porque

de los ingresos públicos que como ustedes recuerdan también era menos que exigua hizo necesaria la adopción de determinadas medidas económicas que ayudaron a sentar las bases de la recuperación económica pero también dicho de una manera llana hacía falta ingresos para que

que los servicios públicos pudieran seguir prestándose esto creo que es un análisis

carente de matiz político a través del real decreto ley veinte barra dos mil doce

se procedió a aumentar los tipos de iva en línea con lo señalado

de la comisión europea que mantenía entonces y supongo que lo sigue manteniendo ahora la necesidad de que españa elevara en su momento

para alinear nuestro país con el resto de socios europeos donde el tipo medio de iva está entre el quince por ciento y veinticinco por ciento dependiendo de los países

por ciento fue a partir del uno de septiembre del año dos mil doce cuando el tipo

en el ámbito cultural experimentó el incremento objeto hoy de debate también

al diez por ciento cuando estaba en el ocho por ciento incluyendo a entradas a bibliotecas archivos museos galerías de arte privadas

nos parece importante recordarlo aplicable a libros a periódicos

del cuatro por ciento siguieron pasando los años las circunstancias económicas también continuaron evolucionando

se introdujeron dos modificaciones notables

concretamente con el tipo de impositivo que afectaba a las importaciones de objetos de arte antigüedades objetos de colección etcétera es verdad que la subida del iva cultural una de las medidas más cuestionadas en esta legislatura ha sido una de las medidas más rechazadas no solo por el sector no solo por los grupos políticos de la oposición

sino que también podemos convenir y podemos llegar al acuerdo de que es una de las medidas

más rechazados por el conjunto de la población nosotros queremos decirles con toda franqueza que no nos gusta

esté en el veintiuno por ciento y así lo hemos reflejado en la enmienda que hemos presentado nosotros queremos manifestar con toda franqueza que queremos

aplicado a estas materias por debajo del diez por ciento y nosotros queremos decirles que estamos políticamente defendiendo allí donde tenemos oportunidad y en esta tribuna también el principio de que

ninguna actividad cultural tampoco el cine tampoco el teatro deben de tener un iva de estas características porque no solo se ve afectada la industria que también

sino que se ve afectado el consumidor

que en momentos de especial dificultad económica hubo que tomar difíciles decisiones económicas por parte del gobierno y nosotros creemos que hoy que la situación económica objetivamente ha mejorado y objetivamente está mejorado hay que rectificar

concretamente en esta del iva aplicado a productos culturales

hemos presentado la enmienda y también quiero decirles

que las informaciones de prensa son eso informaciones de prensa muy veraces porque tenemos afortunadamente una prensa con una capacidad de saber muchas veces más

y yo confío nosotros confiamos en que ese anuncio reflejado en un medio de comunicación se materialice lo antes posible muchas gracias

hace más de un año efectivamente esta cámara decidió instar al gobierno de españa a que lo devolviera a su valor reducido

el gobierno del partido popular y hoy el

entiendo que sigue sin resolverse dos años después por lo tanto señor sémper lo de si son noticia de prensa o no si son galgos o podencos da igual

porque si no no hay nada que hacer bueno pues a ver cuándo porque llevamos toda la legislatura diciendo que el señor rajoy lo ha dicho varias veces y no lo ha bajado y yo creo que con estas cosas no se puede jugar o uno sale en el boe

porque todo lo que está ocurriendo el desastre del sector cultural

y nada más es verdad que este debate hace más de un año tuvo yo creo que un trascurso más aplicado al objeto que nos interesa o que nos debería interesar que es que el iva cultural perjudica al sector de la cultura a la industria cultural y

todos tratar de que salga aprobado algo que trate de corregir esa situación sin embargo hoy hay una dispersión enorme de posturas que estando de acuerdo en teoría todos todos no menos

la faltade acuerdo la forma en que se han redactado algunas enmiendas la forma

el problema lleva a que no sea posible probablemente hoy a acordar

se está tratando de poner por delante el interés político de cada partido respecto

postura ante la ciudadanía en problemas más generales que tratar de solucionar el asunto

con más detalle luego el caso es que el sector cultural y no voy a incidir mucho porque se han manejado datos y lo conocemos todos sí está muy golpeado

el gobierno del señor rajoy ha ido cayendo las posibilidades de supervivencia porque han disminuido

ha disminuido el pequeño margen de beneficio que les permite sobrevivir porque

si se mantienen las entradas ya está ganando un trece por ciento menos pero si además

tienen que bajar las entradas para mantener espectadores está ocurriendo por ejemplo como con el cine que han tenido que promediando descuentos ofertas semanales y tal disminuir de hecho en promedio un nueve por ciento el valor de la entrada trece por ciento más nueve por ciento un veintidós por ciento menos lo que lleva

porque se están perdiendo miles de puestos de trabajo y están cerrando cientos de empresas y eso también está ocurriendo en euskadi eso que es cultura no es algo inocuo afecta a la calidad de vida afecta

algo que todos los gobiernos y administraciones deberían de defender que es el valor de la cultura como algo que pertenece a la formación de la persona

facilita la convivencia y la riqueza social la constitución es un mandato constitucional dice claramente que los poderes públicos promoverán y tutelarán promoverán lo que significa incentivar de alguna forma económicamente

el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho

y el gobierno del partido popular está haciendo todo lo contrario

estamos hablando de un derecho ciudadano protegido constitucionalmente que el gobierno popular está atacando desde que llegó pues bien

lo que incide también en perjudicar la democratización de la cultura y eso también es fundamental el que tiene menos recursos es el que deja de ir

un factor más en esta iniciativa que es equiparar

del libro en papel en cuanto a las enmiendas por destacar algún elemento principal

no podemos estar de acuerdo con las enmiendas de pnv

en los tres casos por distintos motivos en el caso de bildu está claro

su objetivo en un escenario de política general con orientación hacia la independencia y eso es lo que prima es decir caminar a la independencia tener competencia plena en ese sentido

orilla lo que es ahora mismo la solución del problema que nos ocupa que es yo creo a lo que deberíamos de centrar el debate en el caso

plantea lo que aprobamos hace años que fue iniciativa del gobierno socialista pero

introduce un factor que introdujo también en aquella ocasión y es que aquí apoyemos hoy que la comunidad autónoma tenga capacidad normativa sobre el iva

las diputaciones tienen capacidad para recaudarlo para modular pero es verdad que no tiene capacidad normativa la cuestión es

como impuesto eso tiene un problema muy grande para empezar de carácter práctico el iva está relacionado el que pueda funcionar o no con la unión europea

si un impuesto de carácter indirecto

se podría dar el caso de que podríamos

de importaciones yo que sé como el petróleo hidrocarburos importaciones de ese tipo que aunque van

no solo a la comunidad sino al resto de españa recaudaríamos nosotros si se baja todas las que vienen para españa entrarían por aquí eso la unión europea

inmediatamente como una competencia desleal que no permitiría además hay una razón conceptual en

de armonizar los impuestos indirectos para evitar precisamente esa competencia desleal en un espacio europeo

dentro de un mismo estado esto

en sentido opuesto tenemos una complejidad técnica

en este asunto que para discutirlo lo que sería deseable si la intención fuera funcional y no meramente política

en una iniciativa muy concreta sobre el iva cultural

pretender que se discuta en profundidad con toda la complejidad técnica que tiene en el contexto que estoy describiendo

de ese mensaje que alcanzar una consecuencia práctica real que además ayudara al iva cultural que es lo que nos ocupa hoy y por si acaso recordar

todos los años con el estado nos sale favorable y que hay grupos emergentes políticos que están cuestionando cada vez en mayor número el concierto económico y que al final acuerdo comisión mixta o no la modificación

parlamento español es decir que algo que tenemos que funciona muy bien de lo que estamos orgullosos

un pacto al que habría que entrar

nos parece demasiado riesgo un resultado

para estropear algo que no tenemos necesidad de tocar por eso yo pediría

y la enmienda del partido popular merece que en la réplica le dedique un buen tiempo

ikuspuntutik ezertarako balio como digo estando de acuerdo con el contenido de la propuesta y de la enmienda

hay que decir que estamos ante una iniciativa que no defiende la cultura

sabe que no tiene recorrido alguno y además porque rechaza el camino que garantiza el resultado positivo

estamos ante una iniciativa que además de reiterativa nace muerta y lo sabe el proponente nace muerta no por el resultado que pueda obtener hoy sino porque

a lo que aquí salga puesto que tenemos el antecedente del acuerdo de este parlamento del año dos mil trece

más el añadido de la enmienda del grupo euzko abertzaleak y de nuestro grupo hoy además de reiterar

se vuelve a rechazar el único camino que daría viabilidad a lo que se está proponiendo y se vuelve a rechazar por los mismos grupos la petición de convenir

el impuesto de valor añadido no es comprensible dicho rechazo y menos a la vista de lo acaecido con el acuerdo anterior

y vista la posición de los grupos de esta cámara lo único que garantiza que se

sea de nuestra competencia queda manifiestamente claro que si así fuese

ya estaría rebajado tal y como se propone por lo tanto el rechazo no tiene explicación y deja claro

de quienes lo ejercitan no es más que puro postureo

con respecto al partido popular el partido popular ha dicho que va a hacer y parecía que estaba hecho pero la cuestión real es que no se ha hecho la realidad no hay otra con respecto a lo que decía el señor reyes nosotros no vemos ningún problema con el tema de la competencia del iva

no es problema como se demuestra con otras transferencias y no plantea en nuestra opinión problema alguno con el concierto económico ningún problema

por lo tanto consideramos que no hay base para oponerse

nuestra posición respecto a su propuesta es que la misma no mejora absolutamente en nada nuestra propuesta porque en primer lugar es una obviedad

en segundo lugar porque este país necesita el máximo de competencias

para conseguir el mejor estado de bienestar posible de la ciudadanía vasca y en tercer lugar porque su propuesta nos saca precisamente de este debate del día a día

que claro que es un debate necesario pero que acordamos sustanciarlo en la ponencia de autogobierno sí le voy a hacer un par de consideraciones al mitin que ha realizado contra el pnv

sumisamente todo lo que les exigen allí donde gobiernan lo que hacen con este tipo de discursos es engañar y desmovilizar a la ciudadanía cuando exige a las instituciones gobernadas por el pnv que hagan lo que ustedes no hacen diciendo que no es una cuestión de legalidad sino de actitud política

falso es profundamente desmovilizador porque quitando a los convencidos ideológicamente cómo vamos a justificar la necesidad de un nuevo estatus si ya tenemos competencias suficientes y posibilidades para alcanzar nuestros objetivos si para evitar las imposiciones e invasiones competenciales del gobierno de españa basta

es suficiente con lo que tenemos esto es lo que ustedes transmiten a los que no son de su cuerda ideológica y lo hacen a sabiendas de que no es real

pero es que además y se lo tengo que decir son ustedes los más sumisos cumplidores de la legalidad española y los que nos exigen a los demás

no hacen y lo voy a dejar aquí lo voy a dejar aquí porque creo en la colaboración más que en la confrontación pero sí que le advierto que ya de falsas imputaciones al partido nacionalista ya vale eskerrik asko

sí gracias presidenta se agradece que haya una mayoría parlamentaria que haya puesto de manifiesto hoy aquí

en el conjunto de españa e ir incluso hacia una armonización europea sobre todo en fin hay un acuerdo en lo primero en la necesidad de reducir el iva

que finalmente se hayan encontrado entre nacionalistas principalmente yo sí que agradezco y valoro que haya una mayoría parlamentaria también en esta cámara que

de mandar al gobierno de españa esa decisión de reducir el iva

desde luego me ha gustado más la intervención de hoy de sémper que la intervención que realizó el señor damborenea hace algunos meses le he visto más favorable a la reducción

el señor sémper ha llegado a decir que no le gusta

y ha dicho que nosotros ha dicho somos favorables a la reducción

e incluso ha dicho que nosotros compartimos la iniciativa planteada cuando ha dicho nosotros no sé exactamente a quién se refería si al conjunto del partido popular o al pp vasco o al pp guipuzcoano pero en todo caso parece que

no fue beneficiosa y que desde luego a día de hoy corresponde urgentemente al gobierno impulsar esa

sin embargo el señor sémper nos ha hecho un relato histórico y un análisis de la situación económica que nosotros no compartimos nosotros pensamos que los bienes culturales no son como les demás merecen un tratamiento

independientemente incluso de la situación económica en la que nos encontramos pensamos que los bienes culturales tienen que tener un tratamiento diferenciado distinto porque estamos hablando y cultura es algo esencial para el conjunto de la ciudadanía por lo tanto esa pretensión de pretender unir la situación económica en la que nos encontrábamos hace algunos meses con esa decisión de incrementar el iva cultural

equivocada y evidencia también una visión mercantilista de la política estamos hablando ya digo de bienes culturales y por lo tanto los bienes culturales no son como los demás y desde luego no pueden ser considerados de la misma forma que los bienes de lujo

pero es que yo creo que ya andan tarde y en todo caso la pregunta es cuándo van a bajar

y por otro lado si ustedes van a votar finalmente esta transaccional porque sería un paso interesante que el pp vasco inste también al gobierno de españa a bajar ya

yo creo que ustedes lo que deberían hacer es votar a favor de la transaccional

como se ha dicho perjudica al sector perjudica

perjudica a la economía perjudica el empleo perjudica al consumidor y lo que es más importante perjudica a la cultura

en la propia constitución española por lo tanto yo pido a los grupos que traten de diferenciar la situación económica o la fiscalidad que pueda afectar a otros bienes con este asunto del que estamos hablando hoy que es fundamentalmente el asunto

en ningún caso estuvo justificado el incremento de ese impuesto

al empleo perjudicó al sector y además alejó a la ciudadanía de la cultura y por lo tanto lo que interesa es corregir eso cuanto antes

yo sí veo elementos positivos en el posicionamiento de otros grupos lo he dicho está bien que haya una mayoría de grupos que defiendan

usted parece que no ve ningún tipo de elemento positivo en ninguna enmienda ni en ninguno de los planteamientos realizados por los diferentes grupos y nos ha acusado de

nos ha dicho que esta iniciativa nace muerta y que esta iniciativa no tiene recorrido alguno yo creo que es importante lo que diga este parlamento señor arieta a mí me parece que este parlamento es importante por qué dice usted que esto es simple postureo y que no vale para nada acaso cuando aprobamos determinadas iniciativas en este parlamento al gobierno vasco a llevar determinadas actuaciones estamos también realizando puro postureo o perdiendo el tiempo a pesar de que estamos comprobando día sí y día también

yo creo que es importante el paso que pudiera darse hoy por eso yo pido especialmente a los grupos nacionalistas que olviden sus reivindicaciones nacionalistas

el bien común y el asunto fundamental del que se está tratando hoy que es la reducción

es profundamente anacrónico y reaccionario estamos hablando de ir hacia una fiscalidad única

nos parece por lo tanto absolutamente fuera de lugar que otra vez los nacionalistas antepongan sus soflamas nacionalistas sus reivindicaciones nacionalistas a lo que es la cultura algo que debería de unirnos a todos por eso yo

en quince segundos para que entre todos seamos capaces de pedir al gobierno de españa la reducción

en el debate de hoy y creo que deberíamos ser capaces de estar a la altura de las circunstancias y

dejen por un día sus reivindicaciones nacionalistas
dejen por un día esas reivindicaciones gracias eskerrik asko maneiro jauna